buenos días a todas y a todos utilizo este turno para alzar la voz ante la pretensión de eh bildu de que

pueda ser senador español y por lo tanto representante de los ciudadanos vascos o españoles a nosotros esto nos parece ciertamente un insulto

abogado de etarras comisario político de la banda terrorista según el etarra arrepentido latasa

por integración en eta en fin este es el modelo de ciudadano vasco que los representantes de eh bildu quieren que nos representen al conjunto de los ciudadanos vascos y

un insulto que es un insulto al común de los ciudadanos que es un insulto a la sociedad democrática y en concreto que es un insulto

es una falta de respeto y creo que es una provocación creo que eh bildu vuelve a retratarse nuevamente hoy aquí en este pleno sobre lo que es representa por un lado sigue sin condenar a eta sigue sin exigir su disolución incondicional y definitiva

sigue hablando de presos políticos es decir justifica las acciones criminales de la banda terrorista eta y finalmente además de criticar cuando se producen detenciones de miembros de eta además de todo eso nos presenta

presunto candidato a senador a nosotros nos parece como digo un disparate

en silencio y por lo tanto no estamos dispuestos a en fin a no decir nada ante este nuevo insulto a la sociedad democrática nos parece éticamente inaceptable lo que aquí se va hacer y por eso hemos tomado el turno

sobre el dictamen referente a los candidatos a senadores que por lo demás respectos al resto de candidatos a senadores lógicamente no tenemos

nada que decir no tenemos nada en contra de todos ellos pero

al candidato propuesto por eh bildu insisto insultan ustedes nuevamente a la sociedad democrática y nosotros queremos

señorías tomo la palabra para explicar la posición del grupo parlamentario popular con respecto a este dictamen y comenzar diciéndoles

ante la osadía y la falta de sensibilidad de bildu a proponer

como senador español un hombre identificado acusado por pertenencia a eta e identificado por

y los presos es imposible no indignarse cuando ayer se cumplían dieciocho años del asesinato de gregorio ordóñez hombre que se sentaba parlamentario que se sentaba en esta cámara ni entonces criticaron tuvieron la gallardía de criticar aquel asesinato hoy además nos plantean

a un miembro de la banda que le asesinó no hemos llegado hasta aquí no hemos sufrido tanto para aceptar para que aceptemos como normal señora mintegi lo que ustedes hoy nos plantean no hemos sufrido tanto para aceptarlo como normal

intolerable este nombramiento es toda una declaración de principios por su parte de lo que

son y además quieren seguir siendo y hoy no solo votamos a tres senadores

estamos votando una forma de entender el pasado y estamos también votando una forma de proyectar un futuro el futuro de euskadi y ustedes no solo callan

ustedes no solo no responden por qué hasta hace un año asesinar tenía justificación y hoy ya no

no solo no se suman a la mayoría de vascos que queremos vivir sin la amenaza vigilante de la existencia de eta ustedes no solo se suman a la mayoría de vascos que creen que nunca ni un asesinato de un policía nacional ni un ertzaina ni un periodista ni un niño ha tenía ninguna justificación

hoy vienen aquí a regodearse en su silencio y plantearnos que quienes fueron

sean también protagonistas del futuro de euskadi sin ningún tipo de enmienda y ustedes solo ustedes

y al dolor ustedes y solo ustedes con la ausencia de autocrítica cometen y se convierten también en parte de ese

paradójicamente reconocer incluso lo que algunos miembros de eta ya arrepentidos reconocen

y claro ahora nos presentan como senador a un presunto miembro de la misma banda

y a fernando buesa entre otros miren tenemos una tarea ingente

que es construir las bases para que el futuro de euskadi

esa es parte de nuestra inmensa responsabilidad pero ese futuro ese futuro diferente solo se podrá construir en convivencia si dejamos claro que en euskadi asesinar y amenazar nunca ha tenido sentido si dejamos claro que en euskadi

no aceptamos el borrón y cuenta nueva porque no podremos construir nada bueno a futuro si pasamos esta página con la sensación de que asesinar ha tenido algún tipo de justificación y este nombramiento

no solo pretende un borrón y cuenta nueva este nombramiento lo que pretende es ser un ejemplo de lo vasco

en esa actitud y les voy a decir una cosa ni habrá ni hay ni habrá

y téngalo claro señora mintegi nombramientos como el de hoy les retratan

como senador como representante de los vascos en el senado de españa es una ofensa por su puesto que sí a las víctimas del terrorismo y a su memoria claro que si pero es una ofensa también

y es más es una ofensa a lo vasco y a los vascos porque no queremos sentirnos representados no nos sentimos representados y no nos representan tipos

pero es una indecencia y por eso les anuncio señora presidenta que el grupo parlamentario popular no va a participar en esta votación

de enérgico rechazo ante lo que ustedes plantean y señora mintegi hoy siguen representando la etapa

pero lo que para nosotros es aún peor es que no quieren representar ninguna otra cosa muchas gracias eskerrik asko semper jauna besterik gabe

bai berrogeita hamar ez abstentzioak resultado de la votación cincuenta y cuatro

en resumidas cuentas eh bildu lo está diciendo desde la campaña

para que no se produzca ni un solo desahucio más pondremos todo nuestro empeño en ofrecer alternativas a las familias que han sido desalojadas

de forma activa y decidida a las entidades financieras y a las administración

y del acceso de la vivienda esta es la razón por la que

ha sido nuestra primera iniciativa parlamentaria hau lehen urratsa da legeak aldatu bitartean finantza erakundeek

desde el año dos mil ocho se ha venido cobrando muchas víctimas

a los que nos dedicamos a la gestión de lo público y que representamos a los ciudadanos de este país son las víctimas de los desahucios porque

igualitaria hay una parte de la sociedad que está soportando la mayor parte de los esfuerzos y otra que lo hace de forma muy colateral además las leyes vigentes no generan una posición de igualdad a la hora de tratar de resolver los problemas generados por el sobreendeudamiento el lecho

algo básico desde tiempo inmemorial forma parte del núcleo de la dignidad de las personas es un derecho consagrado en nuestra constitución y recogido también en la declaración universal de derechos humanos nuestro sistema no garantiza a día de hoy que los desahuciados puedan encontrar un techo los ciudadanos están contribuyendo a través de los impuestos a recapitalizar

en este sentido este parlamento como representante de la ciudadanía vasca tiene la legitimidad suficiente y necesaria para pedir que bancos y cajas

a tratar de paliar las situaciones sangrantes que se producen a enviar al conjunto de las instituciones vascas un mensaje claro se deben poner todos los esfuerzos posibles para lograr que las personas desahuciadas no entren en el campo de la marginación por eso

tiene dos partes claramente diferenciadas una primera dirigida al gobierno de españa que es evidentemente quien tiene en su mano la competencia para modificar el marco legal y conseguir que la legislación española finalmente se adapte a la europea

y la última advertencia nos llega desde el otro lado del océano nos llega desde el defensor del pueblo de ecuador nada menos que ha recurrido la legislación hipotecaria española ante el tribunal de estrasburgo

pueden encontrar todos ustedes todas las normas que son necesarias cambiar para poner fin a esta situación de desprotección la ley hipotecaria la ley de enjuiciamiento civil la de regulación del mercado hipotecario

pero además planteamos que en el panorama actual se puede y se debe explorar la aprobación de una norma legal

que permitiera una moratoria en el pago de los prestamos de la vivienda habitual cuando la razón del impago sea la situación del desempleo su objetivo es que no se inicie ningún procedimiento de ejecución ni judicial ni extrajudicial una norma así supondría un esfuerzo social para que no se excluya a familias enteras entre todos con recursos públicos

y contribuido al fondo de reestructuración bancaria en comparación con eso el esfuerzo

y las entidades financieras debieran afrontarlo como una aportación suya a la crisis esto con respecto a lo que esperamos de los cambios normativos y lo que pedimos

cosas concretas por ello planteamos fundamentalmente desde diferentes frentes la protección de las personas que han sufrido una caída importante en sus ingresos o que estén en el desempleo

que llevamos de crisis hemos aprendido varias cosas de las situaciones que se producen una la situación de inferioridad en la que se encuentra el ciudadano

otra la pérdida del hogar y el no encontrar una solución a esa situación otra la falta de información temprana

a la hora de conocer con detalle y a tiempo la situación de estas personas que muchas veces se encuentran en nuestro entorno más cercano y también otra necesidad

importante yo creo que es el compromiso serio de todas las instituciones públicas y financieras para encontrar un atajo a esta situación

estas personas en nuestra enmienda proponemos no deberían de ser desahuciadas y de hecho el gobierno vasco en sus últimos seis meses ya empezó a aplicar esta moratoria del alquiler público

desempleo o caída importante de ingresos asimismo instamos no solo a revisar los convenios firmados con las entidades financieras para que no se ejecute ningún desahucio

en euskadi conozcan todos los medios que tienen a su alcance para defenderse también consideramos necesario suscribir un acuerdo con entidades financieras

a poner también una parte importante de su stock de viviendas vacías a disposición de los desahuciados en alquiler social o a no iniciar procedimiento de desahucio alguno estableciendo una moratoria

estas son propuestas concretas que buscan solucionar el problema que nos preocupa a todos porque no hay que olvidar que el número total de desahucios que se ven en las estadísticas judiciales no todas se corresponden a vivienda habitual muchas son locales de negocio fábricas segundas residencias etcétera por lo tanto no estamos hablando de tanto volumen

y por supuesto las instituciones vascas ayuntamientos diputaciones y gobierno junto con las instituciones financieras deben de buscar fórmulas de ayuda a las familias de la misma manera que deben colaborar para establecer ese sistema de alerta temprana que permita atajar la situación a tiempo

y por último recogemos una demanda ética que yo creo que es compartida por el conjunto de la ciudadanía de revisar o incluso romper relaciones financieras con aquellas entidades

los desahucios en definitiva en este año dos mil trece vamos a asistir a situaciones realmente sangrantes

y por lo tanto situaciones como estas se van a dar mucho más

aguantando en una situación límite por lo tanto necesitamos el compromiso de todas las instituciones para trabajar duro y de manera exigente para conseguir un colchón para estas personas y estas familias que más están sufriendo los efectos de la crisis gracias

señora presidenta buenos días a todos efectivamente como se ha dicho aquí la vivienda es un derecho fundamental un derecho recogido en nuestra constitución

es la de muchos ciudadanos que han perdido su empleo que han perdido sus ingresos

su hogar colocándolos y condenándolos en una situación de exclusión social la situación económica que

a un crecimiento exponencial de los desahucios hipotecarios ha dado lugar a una nueva realidad social protagonizada por los deudores involuntarios y de buena fe quienes sufren esta situación se ven envueltos en una espiral de difícil solución ya que a la deuda contraída por el impago de la hipoteca se le suman

de demora se le une que el bien inmueble entregado no cubre en muchas ocasiones la deuda pendiente y por lo tanto ven una situación de insolvencia que les puede condenar financieramente de por vida en euskadi también estamos padeciendo estos desahucios y desde el año dos mil ocho

es por tanto evidente que estamos también ante un problema social de considerable magnitud ante el que cualquier persona con un mínimo de empatía

y ante el que desde los poderes y de las instituciones públicas se debe afrontar con medidas posibilistas y no con meras declaraciones de intenciones

además en las soluciones debe coordinarse la respuesta a la perentoria situación de los afectados con evitar que a futuro se produzca una situación que pueda cerrar la puerta al crédito se debe conciliar el dar respuesta a los casos más extremos y urgentes con soluciones que a largo plazo no impidan el futuro acceso a la vivienda

puso el foco de su preocupación en la estabilidad financiera que no nos parece incorrecto pero lo puso como décimos por encima de la defensa del consumidor

y este no tuvo prácticamente ninguna respuesta eso sí

para limitar las cláusulas suelo y considerarlas abusivas cuando diera lugar a un interés superior al cuarenta por ciento al de la fecha de contratación

seis barra dos mil doce de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recurso

tenía por objeto principal establecer medidas conducentes a procurar la reestructuración de la deuda hipotecaria incluyendo la dación en pago

de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago y cuyos beneficiarios serán las familias que se encuentren situadas en el umbral de exclusión definido este como ausencia de rentas cuota hipotecaria al sesenta por ciento de los ingresos o ausencia de bienes patrimoniales es cierto que en este decreto se establecía un código de buenas prácticas que era de

aunque una vez producida dicha adhesión se torna en obligatorio

en que la alteración de las obligaciones contraídas durante la vigencia de las mismas en perjuicio de una de las partes

que conduce a inseguridad jurídica pero siendo conscientes de que estas medidas debían ser completadas se aprobó el quince de noviembre de dos mil doce un nuevo real decreto el veintisiete barra dos mil doce

el objeto de dicho decreto es parar las consecuencias sociales más agudas de los desahucios en tanto en cuanto se busca una solución definitiva este decreto que no fue apoyado por el partido socialista se ha convalidado en el congreso y está en trámite de enmiendas que vence

en dicha tramitación a las medidas de urgencia que se contienen se unirán otras de fondo que sin poner en peligro la estabilidad financiera den una respuesta al problema social planteado esta nueva normativa cubre la mayor parte de los casos más grave de insolvencia sobrevenida establece una paralización durante dos años de los lanzamientos

aquellas en las que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas en aquellos casos en que la carga hipotecaria se haya multiplicado al menos por uno coma cinco en los últimos cuatro años

y aquellas que tengan un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad y se encuentren en alguna de las condiciones señaladas en el decreto así mismo

destinadas al alquiler con precios accesibles para las personas que han perdido su vivienda el pasado jueves diecisiete de enero se firmó el convenio entre los ministerios de economía y competitividad

las patronales bancarias y las tres entidades de crédito que son las que han aportada

ampliables destinadas a familias de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de su vivienda

por el propio objeto del real decreto lo que constituye la esencia del mismo en él se recogen la solución a los casos de extraordinaria urgente necesidad y otras medidas

por ello tanto durante la tramitación parlamentaria como proyecto de ley como en momentos posteriores se abordarán estos aspectos que modificarán la legislación y pueden establecerse nuevos umbrales para la aplicación del código de buenas prácticas para poder entrar en procesos de reestructuración de la deuda de quita o en su caso de dación en pago y a ello se comprometió el gobierno

dos deben ser los principios rectores que deben inspirar las medidas que las deudas deben pagarse y que la arquitectura hipotecaria debe contribuir al acceso a la vivienda deben y pueden realizarse reformas de calado pero manteniendo este enfoque jurídico y poniendo el acento en la protección de la vivienda habitual y en la distribución de cargas de forma más equitativa entre acreedores y deudores

se abordaron estos aspectos referidos a cuestiones que pueden y deben plantearse durante la

cuestiones referidas a la deuda hipotecaria por una parte a las garantías por otra y por último al procedimiento hipotecario

refiriéndonos a las deudas se pueden plantear medidas que eviten un sobreendeudamiento iniciando un camino hacia un endeudamiento responsable y limitado se pueden establecer así límites legales al endeudamiento tanto desde el punto de vista de ratio de esfuerzo como desde el punto de vista

también se pueden establecer un máximo de incremento de endeudamiento por acumulación de intereses y comisiones de demora con relación a las garantías estas medidas deben llevar

a consecuencia de la subasta a la modificación de la inembargabilidad de las rentas y medidas para aumentar la independencia de las tasadoras aumentando así los instrumentos de control del banco de españa y por último y en lo referido al procedimiento ejecutivo de desahucio que es una fortaleza de nuestro sistema hipotecario

a la directiva noventa y tres barra trece que exige que el órgano judicial disponga de la posibilidad de suspender el procedimiento ejecutivo

todas estas cuestiones deben ser abordadas así se ha dicho en el congreso de los diputados y así aparece en la enmienda que hemos acordado que este grupo ha acordado

y deben ser reconocidas las que lo hagan y deben ser reconsideradas las relaciones en función de la actitud

también el servicio de mediación del gobierno vasco debe ser impulsado sobre todo en su vertiente preventiva y para conseguir fórmulas para que las personas desahuciadas

y también como se ha dicho aquí es necesario la implicación de otras administraciones de las diputaciones y ayuntamientos para dar solución

por ello en nuestra enmienda recogemos que fórmulas de colaboración entre gobierno vasco diputaciones y ayuntamientos con el fin de establecer un programa de ayudas

que afecta a miles de personas y no podemos ser ajenos a dicha realidad social pero las medidas que se adopten como decía también deben ser valoradas para que haya una mayor compensación de las cargas y de la protección de acreedores y deudores

y es de justicia reconocer que el actual gobierno ha sido el único que ha adoptado medidas para tratar de paliar este drama que padecen muchas familias desde luego lo que no vamos es a permanecer callados frente a aquellos que hoy cuando todavía

poco más de un año desde su salida del gobierno claman determinadas soluciones que no solo no aplicaron sino que las rechazaron durante su mandato como la dación en pago o la reforma de la ley de enjuiciamiento civil en materia de ejecución hipotecaria

ante discursos que pretenden dar la sensación de que el problema de los desahucios

como si esta problemática no hubiera existido con anterioridad al dos mil once

de los cuatrocientos mil desahucios ejecutados desde el año dos mil siete el ochenta y ocho por ciento se produjeron durante el mandato del señor

una pena que el defensor del pueblo de ecuador no hubiera presentado esa demanda antes

por qué el partido socialista rechazó la dación en pago durante su mandato por qué no modificaron la legislación en materia de ejecución hipotecaria por qué no aprobaron una paralización y una moratoria de los desahucios qué supervisión realizó el banco de españa en materia de concesión de prestamos y sus garantías de devolución como decía nos encontramos ante un problema de grandes dimensiones

desde la responsabilidad pero no desde la demagogia no desde el oportunismo político no pidiendo unas medidas
enarbolando una bandera que desde luego se tenía arriada cuando se estaba en el gobierno nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

ezabatzeko edo zuzentzeko es por ello que planteamos una modificación de la normativa vigente desde un planteamiento integral

todas las disfunciones existentes y elimine la actual indefensión en los procedimientos hipotecario se aborda la posibilidad de oposición en el prometimiento judicial para que los jueces puedan actuar en los casos de cláusulas abusivas en los contratos o ante irregularidades en el procedimiento de desahucio se propone la regulación de un procedimiento extrajudicial de liquidación de deudas

o la dación en pago y que en el caso de desacuerdo

el deudor de buena fe quede exonerado del pasivo restante para que pueda empezar de nuevo se plantean también

así como el establecimiento de un límite legal a los intereses de demora que no pueda ser modificado en ningún caso y a todo ello se le une la adopción de medidas para evitar el sobreendeudamiento familiar en otro orden de cosas

a mantener en el domicilio a los afectados por un procedimiento de desahucio pagando un alquiler social

viviendas en alquiler social procedentes tanto del stock de las adquiridas por desahucios por las entidades financieras como de las disponibles por las distintas administraciones públicas

se plantea también la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades financieras para establecer un programa de ayudas a los más necesitados

si la dación en pago de facto es un hecho desde el convenio de colaboración financiera de dos mil once

se propone también la mejora del tratamiento de las plusvalías en los casos de desahucio o

se plantea una modificación normativa que es la clave para la resolución del problema porque de otro modo solo se estaría hablando de aplazarlo y probablemente de que con el paso del tiempo se vaya agrandando pero no solo es eso sino que así mismo se plantean importantes medidas en nuestro propio ámbito institucional

y también medidas encaminadas a evitar la pérdida de la vivienda o el mantenimiento de la misma mediante el pago de un alquiler social implicando para ello tanto a las instituciones

es una propuesta de muchísimo calado pero que con el esfuerzo de todos consideramos posible su realización

estamos oyendo todos los grupos décimos lo mismo claro se preguntarán que si esto es así por qué hoy hay dos enmiendas de transacción y no una

en cuanto al partido socialista tengo que decir que no firman nuestra transacción porque quieren más concreciones es decir que ahora demandan

decían que no era posible vamos a ver cuáles son esas concreciones que no se recogen en nuestra enmienda de transacción y que justifican la retirada de la misma del partido socialista hoy nos plantean primero

que están bajo la responsabilidad del gobierno vasco sin embargo el gobierno anterior respondiendo a una pregunta parlamentaria sobre los desahucios tramitados bajo la responsabilidad del gobierno vasco

que la gestión del parque público de vivienda en alquiler obliga a tomar decisiones que en muchos casos no tienen que ver con la insolvencia sobrevenida al objeto de garantizar su viabilidad económica y social de este modo el gobierno alokabide y bizigune

iniciaron quinientos treinta y cuatro procedimientos de desahucio y realizaron doscientos setenta y ocho lanzamientos estos datos se pueden ver en la respuesta a una pregunta al respecto

si miramos a los motivos los motivos que dicen son

y prestaciones estables que no han variado impagos de unidades convivenciales con ingresos demostrados para hacer frente a las rentas de este tipo de parques ya de por sí

porque va por esta línea sin embargo ahora se nos plantea la transacción paralizar inmediatamente todos los desahucios

ya nos dirán a ver luego también se plantea un alquiler social

y que no sería superior al quince por ciento de sus ingresos resulta que con el gobierno del partido socialista los alquileres se fijan también en función de los ingresos familiares de igual manera pero han ido en una orquilla que van entre el veinte

máximo de dichos ingresos familiares como renta atribuible

se nos plantea el quince por ciento máximo claro por qué hoy es posible

es el gobierno no han cambiado las circunstancias en cuanto

en la proposición no de ley ni siquiera se alude a la raíz del problema que es cambiar la deficiente legislación por lo que no se comprende bien cómo se pueden solucionar los problemas si no se ataca la raíz de los mismos las propuestas

así realizadas no se pueden considerar más que meros parches que atacan los síntomas pero no la enfermedad

de la transacción acordada con el partido socialista parece que estos grupos no se creen que el problema se pueda solucionar de raíz que solo es posible medidas paliativas

tras un lanzamiento por desahucio por ello relegan a un segundo plano

el marco normativo que termine con la actual situación injusta que es a nuestro entender la causante

gracias presidenta buenos días de nuevo buenos días señor lehendakari efectivamente discutimos un asunto que es de extraordinario interés porque afecta al drama de los desahucios a miles de ciudadanos de manera directa

estar abocados directamente al drama de los desahucios pues lógicamente observan

hay que resolver nos encontramos en una situación de terrible crisis económica

del paro de graves dificultades económicas de incremento de la pobreza de incremento de la desigualdad de ejecuciones hipotecarias de más pobreza de desahucios como último estadio de la crisis económica y las injusticias que miles de personas están padeciendo dramas personales dramas familiares

atrapadas por una burbuja inmobiliaria impulsada y fomentada no lo olvidemos por los poderes públicos una burbuja inmobiliaria impulsada y fomentada por los últimos gobiernos de españa y

diciendo mientras ocurría todo esto se

con dinero publico con dinero de todos los españoles nosotros pensamos que hay que rescatar a los ciudadanos y que la mejor manera de rescatar a los ciudadanos es como ya se ha expresado por algún portavoz modificando razonadamente las leyes injustas que benefician a las entidades financieras y perjudican a los ciudadanos y ciertamente es curioso que la iniciativa original de eh bildu no proponía ni una sola modificación legal cuando resulta que es la cuestión principal hay una serie de leyes injustas que hay que modificar y desde aquí lógicamente volvemos a instar al gobierno de españa

esas leyes injustas salir a la calle y protestar está bien y es indispensable sin ningún tipo de dudas pero además de eso hay que acompañar estas protestas con modificaciones concretas de leyes como digo claramente injustas

se han negado reiteradamente a impulsar reformas legales que evitaran situaciones injustas y dramas personales y familiares se han negado reiteradamente a poner en marcha al menos medidas paliativas para hacer frente al drama de la burbuja inmobiliaria y los desahucios

repaso de todas las alternativas a los desahucios que tanto el gobierno del pp como el gobierno

limitar la concesión de créditos para adquirir una vivienda a través de determinadas medidas contra

crear un parque público de viviendas conceder en los contratos de compraventa promesa u opción de compra o permuta un plazo de quince días hábiles a partir de la fecha efectiva de la firma del documento para desistir

eliminar las cláusulas abusivas como los intereses moratorios excesivos los avales o garantías desorbitadas o las comisiones y gastos de estudio para la concesión del prestamo la denominada solución concursal planteada en su momento por upyd

siga manteniendo de por vida una deuda con el banco

protección del domicilio en caso de embargo para evitar que aquellos que no puedan pagar la hipoteca se queden en la calle diversos grupos presentaron distintas iniciativas en este asunto desde un alquiler a precio fijado hasta la liquidación aplazada

por parte de los grupos mayoritarios de la cámara por parte del partido popular y del partido socialista

nosotros mismos presentamos hace casi un año una proposición de ley relativa a la dación en pago y la protección de las personas físicas insolventes que fue rechazada por la mayoría absoluta del pp y que no fue tomada ni siquiera

modificar las ejecuciones hipotecarias para evitar la sangría y drama social de los desahucios y ante las crecientes voces críticas también se ha solicitado que el juez pueda establecer periodos de carencia en el pago ampliaciones del plazo de amortización

y quitas de la deuda como digo estas son solo de las interesantes propuestas que se han venido planteando en los últimos años en el congreso de los diputados y que tanto el partido popular como el partido socialista obrero español

reiteradamente por lo tanto queda dicho que las situaciones injustas provocadas por leyes injustas se solucionan o al menos palian modificando esas leyes injustas y es lo que nosotros proponemos a través de esta transaccional que efectivamente hemos firmado con el grupo nacionalistas vascos y con el grupo popular en nuestro caso concreto

hemos propuesto la modificación de la ley concursal en el congreso de los diputados la modificación de la ley hipotecaria la modificación de la ley de enjuiciamiento civil

y otras leyes asociadas a esta presentamos en su momento una proposición de ley para introducir la dación en pago y la protección de las personas físicas insolventes hemos presentado también la iniciativa de fresh start que ya existe en otros países y la promoción hipotecas de responsabilidad limitada todo esto ha sido reiteradamente rechazado en los últimos años en los últimos meses esta es la realidad de los hechos también presentamos y defendimos en su momento una proposición no de ley sobre la necesaria limitación de los intereses de demora

a los deudores hipotecarios y hace escasamente mes y medio o dos meses cuando el gobierno de españa actual presentó el real decreto ley del quince de noviembre de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios a pesar de que como ya dijimos en su momento

claramente insuficientes votamos a favor de su convalidación en lugar de hacer demagogia para inmediatamente después presentar una batería de enmiendas que tuviesen como objetivo mejorar la ley

en concreto la creación de una comisión nacional de endeudamiento o la adopción de medidas legales para que quienes resulten despojadas de su vivienda puedan mantener el uso de la vivienda por un plazo mínimo de tres años mediante un contrato temporal de comodato o un arrendamiento

alquiler social o las medidas legales necesarias en el código civil la ley de enjuiciamiento civil y la legislación hipotecaria a fin de permitir que quien lo desee pueda adscribir

de inembargabilidad de la vivienda habitual también en el parlamento vasco hace hoy exactamente

sobre la regulación de la dación como regla general de extinción del crédito

hay muchísimas cosas que se podrían haber hecho y que no se han hecho hasta ahora y que nosotros esperamos que puedan hacerse a partir de ahora desde luego este debate no termina hoy y además de aprobar esta enmienda transaccional con el grupo popular y con el grupo nacionalistas vascos seguiremos instando al gobierno central a que lleve a cabo todas estas modificaciones legales para corregir leyes y estaremos vigilantes para ver si efectivamente esta enmienda transaccional la cumple o no el gobierno vasco en todo caso insisto si hay dinero público para ayudar a las entidades financieras con más razón

de esta burbuja como decía el grupo proponente nos proponía inicialmente algo así como una serie de parches pero no proponía ninguna modificación

de ahí nuestra enmienda y de ahí nuestro acuerdo con el grupo nacionalistas vascos y con el grupo popular creo que hemos presentado en esa transaccional una batería de iniciativas

ambiciosa y clara que puede solucionar este gravísimo problema como digo esto no acaba aquí seguiremos estando vigilantes para ver lo que hace

ver qué hace el gobierno vasco ciertamente llama la atención

socialistas que no ha querido sumarse voluntariamente a este consenso y a preferido unirse a eh bildu no tanto a sus medidas que yo creo que ni las cree ni las comparte ha optado por

para defender una serie de medidas que ellos posiblemente no comparten y que desde luego

la responsabilidad en el gobierno lo único por lo tanto que le interesaba al grupo socialista

unas iniciativas que no solamente no son rigurosas que no solamente no van a la raíz de los problemas sino que muchas de ellas o todas ellas

ni cuando estuvieron en el gobierno de españa ni cuando estuvieron en el gobierno vasco pero en fin allá cada uno con su nueva actitud política nosotros estamos orgullosos de esta transaccional que hemos firmado con el grupo nacionalistas vascos y con el grupo popular

y que sea un paso importante para acabar con esta lacra de los desahucios y de las situaciones injustas

la verdad es que algunos de los grupos son bastante previsibles a la hora de utilizar argumentos yo señora llanos no tengo ningún inconveniente porque ni mi grupo en euskadi

han dudado ni un ápice en reconocer sus errores a la hora de no hacer los cambios normativos cuando debieron y por lo tanto creo que eso

pero estamos haciendo política en euskadi este es el parlamento de euskadi por lo tanto yo creo que tenemos que centrar el debate en qué es más allá de la petición de los cambios normativos

porque veintinueve decretos legislativos en apenas nueve meses nueve cambios relacionados con la economía también en un tiempo record tengo bastantes esperanzas de que por lo menos en el primer semestre será capaz

las reformas que son necesarias pero en cualquier caso

mientras ha ocupado la responsabilidad de gobernar en euskadi lo dio todo es decir dio un paso que no se había dado y trató de poner en la medida de sus posibilidades

que son personas que tienen en esa vivienda su único lecho y su único techo y

mucho y tuvimos muchas presiones y lo tuve que protagonizar yo en primera persona porque fue mi departamento junto con vivienda y consumo quienes pilotamos

y debo decir que costó mucho pero se puso en marcha de la misma manera creo que por eso esta enmienda transaccional que hemos firmado nosotros lleva medidas concretas porque hay que apoyar al gobierno para que parta de una posición de fortaleza a la hora de negociar con las entidades financieras porque si nos quedamos en lo genérico en lo posibilista como dice usted

y como le decía antes el año dos mil trece pinta bastante negro y nos vamos a encontrar con unas situaciones

querámoslo o no y cuanto antes nos pongamos a la tarea mucho mejor

esas cuestiones antes se alcanzarán pero bueno ustedes han elegido otra cuestión el señor arieta araunabeña yo creo que no se ha leído la enmienda que se ha repartido por parte de los de la cámara porque realmente en lo relacionado precisamente al alquiler

no está tal y como usted lo ha dicho y si quiere luego se lo explico porque tampoco es cuestión de que perdamos demasiado tiempo en esta cuestión nosotros

lo que creemos es que debemos hacer lo posible y lo posible

y debemos exigir al gobierno de españa por un lado que lleve estos cambios legislativos cuanto antes al parlamento y debemos exigir que con la ayuda y el concierto del resto de instituciones vascas planteé soluciones prácticas y fáciles a los ciudadanos que se encuentran en esa situación de insolvencia por que el señor maneiro decía que estaba orgulloso de la enmienda que había firmado pues yo espero que pueda seguir orgulloso dentro de un año cuando lo sometamos al control parlamentario a este gobierno y usted se encuentre que no tiene indicadores con los cuales

hay que tener una serie de indicadores si este es el límite dónde podemos pedir hasta dónde ha cumplido el gobierno y qué objetivos ha cumplido

absolutamente ningún indicador al que podamos los parlamentarios de la oposición

en definitiva el tiempo de lo genérico el tiempo de lo ambiguo ya no hay margen para ello porque es el tiempo de las soluciones y de las respuestas concretas que demandan los ciudadanos que se quedan en la calle
por eso es por lo que el partido socialista ha firmado esta enmienda eskerrik asko mendia andrea

gracias señora presidenta de nuevo se ha dicho aquí

casi me he adelantado yo en mi intervención que no se había hecho nada y se ha tratado de decir somos iguales y que todos hacemos lo mismo y no es así el gobierno de españa presidido por el partido popular ha sido el primero que ha hecho dos decretos de protección de los deudores y eso es hacer cosas concretas

evidentemente nos encontraremos con más casos por eso como decía el señor maneiro es cierto upyd aprobó convalidó ese decreto y ahora llega el tiempo a través de la tramitación del proyecto de ley de ver esas enmiendas que como decía en mi primera intervención en el debate que precedió al decreto

se mostró la disposición a llegar a un acuerdo tanto para aumentar los umbrales de la aplicación del decreto como para hacer las modificaciones legislativas pertinentes en este proyecto de ley o en futuras modificaciones legales que vayan como usted decía y como decía el portavoz del partido nacionalista vasco a la raíz del problema a modificar la legislación eso sí

es hacer una serie de declaraciones de intenciones es no decir que hay que conciliar como yo decía en mi intervención

al que se enfrentan muchas familias que han perdido su vivienda

que no nos hipoteque y nunca mejor dicho a futuro que no impida que en un futuro haya personas que puedan acceder a una vivienda y eso hay que hacerlo conciliable y eso

eso se consigue tomando medidas eso no se consigue con meras declaraciones de intenciones en la enmienda que nosotros hemos presentado se recoge pormenorizadamente una serie de medidas pero claro si nosotros somos previsibles lo del partido socialista su previsibilidad ya raya el esperpento

de la generalidad como ha dicho aquí el tiempo de la generalidad es siempre el tiempo en el que está un gobierno del partido socialista

me alegro de que por fin reconozcan que se equivocaron que se equivocaron cuando permanecieron impasibles ante los cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis desahucios que se produjeron en el dos mil ocho ante los noventa y tres mil trescientos diecinueve que se produjeron en el dos mil nueve

y ante los setenta y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro incoados en el dos mil once cuando

ustedes desde luego poco hicieron era el tiempo de la generalidad a última hora a última hora lo hicieron y cómo lo hicieron eso sí se dedicaron a expropiar a gente a desahuciar a gente a echarla a la calle y yo tengo casos de gente

a hablarme de esos casos desahuciados por el gobierno vasco eso sí a tener viviendas vacías para las que estaban buscando un comprador pero que desde luego no las pusieron a disposición

pero es que como le digo son previsibles el tiempo de la generalidad es el tiempo en el que gobierna el partido socialista

es el tiempo en el que gobierna el partido popular y ustedes en esos sí son previsibles y son auténticos maestros auténticos maestros en no hacer nada cuando están en el gobierno

y por eso no quisieron llegar a un acuerdo y por eso porque en tres días pretendían meter en un decreto lo que no habían hecho en ocho años de gobierno pretendían en tres días subsanar todos sus errores y todas sus vergüenzas y por eso no firmaron el decreto un decreto que como digo contiene medidas específicas de protección

está puesto en marcha y que ofrecía modificaciones posteriores porque como les decía ustedes enarbolan ahora la bandera de la acción pero cuando en su etapa

del gobierno de españa se dedicaron a veranear

se dedicaron a hibernar a no hacer nada como en tantos otros temas dejaron pasar hicieron la política de brazos caídos que ha llevado a la situación actual y piden que otros hagan tanto desde el gobierno vasco como desde el gobierno de españa lo que ustedes

esta enmienda en la que sí que pretendemos hacer cosas hay cosas concretas hay instancias concretas a quien tiene que modificar la legislación y estaremos vigilantes de que lo hagan

el psoe es el partido que quiso vender tres mil viviendas protegidas porque el sistema no daba más de sí en el tema

y el consejero señor arriola aseguró además que decíamos adiós a la promoción de vivienda en alquiler durante los próximos años

con el que han firmado ustedes la transacción por lo tanto

con respecto a la señora mendia tengo que volver a decirle que no he encontrado ninguna propuesta de concreción

lo que ustedes han firmado diferente a las que le he mentado en mi primera intervención

que no está escrito así yo lo del quince por ciento lo veo con una claridad meridiana y creo que sí que está escrito así

ahora si antes eso no se podía hacer y ahora sí se puede hacer cuando lo único que ha cambiado es el gobierno y no ha cambiado

cómo se hace esto decía también la señora

que esto del cambio de normativa en los próximos años que esto tardará mucho y tal precisamente lo que tenemos que hacer es que no tarde que sea urgente nosotros estamos hablando de que se haga

dentro del primer trimestre de este año claro si ustedes lo que dicen es que las moratorias como mínimo tienen que ser como mínimo de dos años lógicamente están diciendo a las claras que ni ustedes ni el partido socialista

de que esta normativa se modifique y entonces el problema lo único que va a hacer es acentuarse porque si no se produce la modificación de las normas la verdad es que esto tiene

muy mala solución por lo tanto no sé el plantear este tipo de cuestiones de con quién has firmado o con quién no has firmado para mí lo que deja a la vista es que se está entrando en una dialéctica en la de izquierdas derechas bajo cuyo manto

al partido socialista que lo cura todo pero en realidad todos sabemos muy bien

no cura nada por lo tanto cada uno
se atenga a las consecuencias eskerrik asko eskerrik asko

eh bildu no ha empezado muy bien esta legislatura

como candidato a senador a un proetarra y en el segundo punto lo que hemos visto es que presentan una proposición no de ley que es prácticamente la nada o sea que les pido que preparen mejor los temas porque desde luego con lo que ustedes proponían en la proposición no de ley original desde luego no se resolvía el tema de los desahucios en absoluto por lo tanto sean más rigurosos estudien mejor los temas y

sean más razonadas que sean más ambiciosas y que vayan a la raíz de los problemas que es que hay que modificar las leyes injustas a ustedes esto les parece voluntarismo ustedes a la propuesta de tratar de modificar leyes injustas le llaman voluntarismo qué proponen que tomemos el congreso de los diputados habrá que proponer la modificación de determinadas leyes ustedes no han propuesto ni una sola modificación legal cierto que luego con la enmienda que han transaccionado

completan la iniciativa pero desde luego no es ni por asomo mejor que la nuestra y desde luego

leyes injustas a impulsar medidas paliativas para acabar con el drama de los desahucios y desde luego esta transaccional mandata asuntos específicos tanto al gobierno vasco como al gobierno central para que tomen determinadas iniciativas concretas y hagan determinadas modificaciones legales y nosotros estaremos muy atentos a que efectivamente esto que mandatamos se cumple

en los próximos meses el grupo socialista tampoco está en su mejor momento ciertamente en fin

lo saben ellos saben que no han movido un dedo para acabar con el drama de los desahucios al revés han votado en contra de iniciativas que tenían como objetivo fundamental acabar con los desahucios y ahora en fin pactan con el grupo eh bildu medidas que ellos mismos descartaron que ellos mismos no aplicaron

es cero eso sí se muestran muy arrepentidos los socialistas están muy arrepentidos de su pasado hacen propósito de enmienda

bien iremos viendo a ver qué es lo que ustedes proponen y siempre que sean cosas serias nosotros no

en apoyarlas si proponen eso sí cosas serias cosas con contenido y cosas argumentadas pero no es el caso mientras tanto quizás igual ustedes en determinados asuntos sobre todo los relacionados con la crisis económica deberían estar una larga temporada en silencio o al menos no mostrarse tan

intentando instar aotros gobiernos a hacer justo a aquello que ustedes no quisieron hacer por lo tanto en fin yo les aconsejo algo más de humildad en los próximos meses

y recuperan la credibilidad perdida en todo caso ya digo esta transaccional

y nosotros estaremos muy atentos a que efectivamente lo que aquí se pone se cumpla gracias eskerrik asko maneiro jauna eztabaida amaituta

del punto tres pues vale

bai está aquí si ya está ya me ha llegado el papel

gracias señora presidenta muy buenos días señorías intervengo en nombre del grupo popular vasco con el fin

no de ley la primera que presentamos en esta legislatura y la primera que hemos querido debatir pero permítanme que comience mi intervención recordando a gregorio ordónez asesinado por el terrorista de eta

así mismo también quiero rendir homenaje a rafael leiva que sufrió un atentado de eta unos días antes ese mismo año en la oficina

así como el resto de víctimas del terrorismo y en especial las setenta y cuatro asesinadas

de enero todas ellas víctimas inocentes

que la misma mañana en la que hemos asistido a la elección de los senadores este grupo parlamentario siente la necesidad de que este parlamento

se pronuncie con claridad en esta materia la pasada legislatura logramos con la participación

restañar viejas heridas porque las teníamos también entre los grupos parlamentarios por diferentes actuaciones seguramente frases gruesas que nos habíamos lanzado unos a otros conseguimos como les decía a través de la ponencia

sentarnos y establecer unas bases para el futuro para el futuro

en el país vasco el partido popular lo consideró positivo y nuestro grupo cree que es necesario que se siga profundizando en su labor

eso se lograba compartiendo unas exigencias democráticas claras

ese era el mínimo común denominador que permitió otras reflexiones una circunstancia que este grupo considera imprescindible

de grupos parlamentarios me gustaría recordar que la creación de esa ponencia y el llegar

de mínimos entre los grupos parlamentarios fue un esfuerzo de todos pero que además también fue un esfuerzo personal de unas personas que demostraron una gran coherencia y que yo creo que les debemos también ese esfuerzo

refiriendo a los tres parlamentarios de entonces aralar que hicieron un esfuerzo de coherencia que todos alabamos y que creo que deberíamos de hacer un esfuerzo para que en esta legislatura pudiéramos mantener

del resto de grupos parlamentarios y defiendo esta iniciativa se lo tengo que confesar con cierto sentimiento de vergüenza

para nosotros debatir si condenamos o no más de ochocientos asesinatos de la banda terrorista eta si mostramos o no nuestra solidaridad con sus familias y si nos comprometemos con su exigencia dignidad y justicia debatir si es legítimo o ilegítimo en democracia imponer con violencia las propias ideas a los otros

por la fuerza de las armas pretendidos derechos colectivos para justificar la violación de inalienables derechos individuales que no es otra cosa que aceptar el estado de derecho como fórmula de convivencia en libertad

y tengo que responder que desgraciadamente sí nos vemos en la obligación de someter a votación esta iniciativa confiando ahora con menos fe

o no la historia criminal de eta porque solo el hecho de que se tenga la duda sobre el resultado de la votación supone introducir

un elemento reaccionario un elemento incompatible con los derechos humanos

de la dignidad de la persona o con la defensa del derecho a la vida de todas y cada una de las personas no se puede relativizar la democracia ni las libertades

y quienes los han vulnerado deben reconocerlo con hechos si quieren llegar a la democracia que eta no se disuelva

una organización dedicada a violar los derechos de todos

o la negativa a exigir su disolución algunos están en una clara estrategia por cierto no nueva de tratar de anestesiar a la opinión pública

retrocediendo así a aquellos tiempos en los que la imbatibilidad de la banda era un tópico

todos lo recordamos era imposible derrotarla había una especie

de los demócratas era mejor renunciar de antemano porque no se podía lograr ese objetivo o hacer prevalecer las libertades frente a los terroristas lo cierto es que afortunadamente

las decisiones políticas y la determinación de los demócratas han contribuido a acorralar a los terroristas porque este cambio de estrategia

pero somos conscientes de que este cambio de estrategia de todo este mundo escenificado de diversas formas no obedece una convicción sincera y firme

ni a la asunción de la responsabilidad que todo ese mundo tienen en ello porque sabemos lo que ha día de hoy dicen sus estatutos

la condena a eta hoy tenían una nueva oportunidad para en sede parlamentaria la casa de la democracia votar la iniciativa presentada por nuestro grupo

pero sé que esto sería pedirles un ejercicio de valentía y de honestidad que está fuera de su alcance de sus hechos esta mañana y de su enmienda

con una manipulación absoluta del lenguaje y confirmarán una frase que leía no hace mucho tiempo

y dictando para durar por ello señorías apelo al resto de grupos parlamentarios en nuestras manos está mantener el listón de la exigencia democrática la política lo que aquí en este parlamento desarrollamos debe estar al servicio de las libertades y por tanto de la derrota del terrorismo y no al servicio de la negociación y la cesión frente al terrorismo

se preste a ser espectador ni coro ni comparsa ni segundón en los montajes que ellos organizan creo que como políticos es exigible

esta realidad que tengamos ese compromiso democrático elemental que es llamar a las cosas por su nombre ya que con independencia de tribunales no tenemos derecho

a esa realidad por ello señorías pido su voto positivo a la exigencia democrática que plantea nuestra iniciativa porque lo contrario afectará a la calidad de la democracia que estamos construyendo y en lugar de hacerla crecer dejaremos que se pervierta

que miraremos al futuro sí pero que seguiremos oponiéndonos a construir el futuro del país vasco de la mano de los terroristas que no vamos a pactar

y sabemos claro que sabemos que resulta incomodo que tenemos que aguantar que nos tilden de enemigos de la paz

qué desfachatez pero sabemos que es nuestra obligación y nuestro deber para lograr una euskadi

evidentemente estamos de acuerdo con la iniciativa original y evidentemente votaremos a favor de ella es cierto que nosotros presentamos una enmienda de totalidad para intentar completar

especialmente el recordatorio el recuerdo de que existen a día de hoy trescientos veintiséis crímenes sin resolver cometidos por eta proponíamos que se incluyera en esa enmienda transaccional que podríamos haber firmado con el grupo popular finalmente no se ha hecho pero ya digo que no tiene mayor importancia porque aquí lo importante es que todos al unísono seamos capaces de

cualquier demócrata es algo absolutamente natural y normal

por lo que parece se va a producir nuevamente una división en este parlamento y por lo que yo intuyo vistas las enmiendas únicamente el partido popular y upyd

una condena expresa clara y rotunda a eta espero que finalmente el grupo nacionalistas vascos y el grupo socialista se unan a esta iniciativa original y efectivamente se condene la actividad terrorista de eta para dejar sobre todo en evidencia quienes son los que no quieren condenar a día de hoy el terrorismo de eta

con el estado de derecho aplicar la legalidad vigente aplicar la constitución española respetar los derechos humanos eso es la convivencia por lo tanto lo que añade esta iniciativa es

en evidencia o desenmascarar a los que siguen a día de hoy unidos a eta y demostrar que más allá de estrategias siguen sin cumplir la ley de partidos y sin aceptar la democracia obviamente me refiero a eh bildu creo que esta es una iniciativa que va a servir para volver a desenmascarar

que en absoluto cumple la ley de partidos porque a día de hoy sigue sin exigir la disolución incondicional de eta y sigue sin condenar toda su historia podemos recordar lo recién dicho por el tribunal europeo de derechos humanos la no condena es fundamental se dijo para ilegalizar pues bien a día de hoy lo cierto es que amaiur bildu y eh bildu siguen sin condenar y siguen sin exigir su disolución incondicional

de miembros de eta y siguen llamando presos políticos a presos que están en las cárceles

perfectamente tipificados en el código penal es decir es una obviedad que amaiur bildu y eh bildu siguen sin cumplir

a la fiscalía a que inicie el proceso de ilegalización de esas formaciones por no condenar a eta a día de hoy no se ha hecho y no parece que vaya a ocurrir en un futuro inmediato porque se sigue regodeando con determinadas actitudes como presentar como candidato a senador

o justificar las acciones cometidas por la banda terrorista eta

nosotros hemos presentado una enmienda que trataba de mejorar el texto original no ha habido un acuerdo no hay mayor problema nosotros votaremos a favor de la iniciativa original

de eh bildu habla de que el parlamento vasco reconozca el dolor y el sufrimiento causado por todas las violencias en euskal herria es decir

del conflicto político para justificar las acciones criminales de eta eta existió porque había un bando enfrente que utilizaba la misma violencia que ella otra vez la gran mentira que nosotros no vamos a permitir esa enmienda también habla de que es preciso conocer la verdad

que existen a día de hoy trescientos veintiséis crímenes cometidos por eta pendiente de resolución de los que nunca dicen nada los miembros de

esa enmienda de totalidad de eh bildu insta a los gobiernos de españa y de francia como a eta es decir

a eta con gobiernos democráticos y esto vuelve a significar un insulto evidente a las instituciones democráticas a la ciudadanía y especialmente

del terrorismo y finalmente dice que hay que buscar acuerdo un proceso para la inutilización de las armas y el desmantelamiento de las estructuras militares

otra gran mentira eta tiene que entregar las armas y no tiene ninguna excusa para no hacerlo

para tratar de seguir condicionando y chantajeando a la sociedad democrática en definitiva

no cambia de actitud eh bildu sigue sin querer condenar a eta eh bildu sigue sin reconocer lo que ha significado eta durante décadas en este país y las barbaridades que ha cometido y por lo tanto sigue sin cumplir la ley de partidos

creo que pedir a eh bildu que condene a eta no es suficiente y los partidos políticos democráticos deberíamos hacer un ejercicio de coherencia mientras que eh bildu no condene la historia criminal de eta

coherente en concreto me refiero a una serie de situaciones que se están dando en los últimos meses en euskadi hemos visto cómo el partido socialista de euskadi ha dado vía libre ha llegado a un pacto presupuestario en la diputación foral de gipuzkoa

y a la deslegitimación del terrorismo y creo sinceramente que es un grave error el señor maroto que no está aquí presente pacta

y no solamente eso sino que cuando llega a acuerdos con bildu dice nada más y nada menos que cunda el ejemplo esto a nosotros nos parece sencillamente un grave error porque son aptitudes que legitiman a amaiur

ellos dirán para qué vamos a condenar a eta o abjurar de nuestro pasado si ya nos tratan incluso mejor que a otras formaciones políticas para qué vamos a condenar a eta si podemos pactar determinados asuntos en el ayuntamiento de vitoria o en la diputación foral de gipuzkoa con partidos políticos

hoy aquí y como lo pienso lo digo en todo caso insisto absolutamente fundamental dejar alto y claro que es

volver a pedir en este parlamento volver a condenar a eta volver a condenar toda su historia y quienes efectivamente no den el paso de condenar a eta quienes sigan legitimando su historia insistimos seguirán incumpliendo la ley

gracias señora presidenta hoy tenemos en parlamento vasco un vez más y ya son bastantes propuesta de condena de eta una condena que se ha debatido en numerosas ocasiones en este parlamento una condena que se ha producido también en numerosas ocasiones

hoy más nos parece una especie de competición entre el partido popular

para ver quién pone más alto el pabellón de la dureza en este extremo no quiero con eso desprestigiar la propuesta ni quitarle mérito

desaparezca pero nos parece que los argumentos están ya

todos hemos dejado claro en numerosas ocasiones cuál es nuestra postura desde luego es evidente y nítida que la postura del partido socialista

pero también pensamos que en este momento más allá de las declaraciones de condena a las que yo anuncio el voto favorable del partido socialista a la suya creemos que además de hacer condenas hay que trabajar firmemente para que esa desaparición definitiva se produzca cuanto antes

creíamos y creemos firmemente que la ponencia de paz y convivencia es un elemento fundamental para trabajar entre todos conjuntamente para hacer posible cuanto antes la recuperación de la convivencia de la normalidad democrática y por supuesto la desaparición definitiva de eta

retóricos que tratan de marcar posición política no lo voy a criticar pero creo que es más útil dedicarse a lo que tiene de verdad

de futuro por eso no vamos a proseguir más en este debate la posición del partido socialista se ha manifestado en numerosísimas ocasiones es más que evidente que nosotros exigimos

la desaparición incondicional de eta por lo tanto votaremos a favor de la enmienda

pero no tenemos intención de participar más en este debate porque nos parece que en esta ocasión tiene mucho más de retórico que de real eskerrik asko pastor jauna

gracias señora presidenta señor pastor yo

sentía cierta vergüenza al tener que presentar una iniciativa de estas características porque considero que este parlamento se ha manifestado

en relación con la condena del terrorismo yo no necesito que el grupo socialista tenga que manifestarse ni tampoco que el grupo nacionalista vasco o que el grupo

a su grupo pero sí que creo que es necesario y es más necesario que nunca y además esto lo hemos comentado ya y lo hemos visto en la legislatura anterior porque una de las razones por las que se creo

fue precisamente porque vimos la necesidad de establecer unos pilares como ha mencionado el señor básicos sobre los que podernos sentar y empezar a hablar

y lo que estamos pidiendo porque también en esos pilares en los que establecimos se hablaba de la condena del terrorismo de eta estamos pidiendo que el nuevo grupo que está en este parlamento porque la legalidad así lo ha establecido también se sume y asuma

porque nos parece que es la base sobre la que realmente podemos construir un futuro

otras reflexiones y señor egibar probablemente lo que

fuimos capaces de hacer algo muy importante porque llegar a un acuerdo de las características como el que llegamos que yo creo que fue

que desde luego nosotros creemos que este pleno debería asumir como propio

y usted lo que hoy nos estaba proponiendo aquí era que

que eta necesita una pista de aterrizaje que necesita saber dónde tiene que entregar las armas que necesita poner de acuerdo a españa y a francia para qué para que no detenga etarras

hay mucho sobre lo que hablar y seguramente habrá muchas cosas en las que no estemos de acuerdo pero hay una básica en la que nos pusimos todos de acuerdo que era

y que no se puede utilizar la violencia para imponer ninguna postura política

lo que estamos diciendo desde el partido popular es que esta legislatura tiene que seguir en la misma dirección y ojalá seamos capaces

pero no podemos rebajar la exigencia y yo hoy no venía aquí pensando que eh bildu iba a apoyar esta iniciativa lo teníamos claro la exigencia está en el resto de grupo parlamentarios en el grupo socialista de euskadi en el grupo nacionalista vasco

porque somos nosotros los que tenemos que marcar en este momento donde está el listón de la democracia y desde ahí empezar a trabajar en la convivencia

de esta tierra y esa es la exigencia y ese es el reto que tenemos durante los próximos años en esta legislatura y muy especialmente el gobierno vasco

después de lo que hemos oído por parte del representante de bildu lo que les tenemos que decir es que tienen un claro déficit de legitimidad democrática ante esta cámara y ante la sociedad

no reconozcan el daño causado por eta tienen ustedes

como para bajar a esta tribuna y poner deberes a los demócratas

porque ténganlo claro ya se lo he dicho en mi primera intervención una cosa es la legalidad

su condición de demócratas que es algo que todavía tienen pendiente cuando hablan de otras víctimas

ponerlas al servicio de su teoría del conflicto

así el sufrimiento de eta difuminarlo equiparándolo a otras situaciones y tergiversando la realidad histórica y social

es en una manipulación absoluta del lenguaje y termino señora presidenta diciendo que el partido popular vasco

y lo haremos con plena legitimidad y con plena convicción

sin legitimidad democrática por muchos votos que ganen porque diecisiete millónes tuvo nada más y nada menos de hitler

omiten la libertad como objetivo de la acción política